la riqueza de las naciones hoy sabemos que la riqueza de las naciones es cada día más la riqueza

los países más ricos son precisamente los que más invierten en investigación y desarrollo

precisamente porque han invertido más el conocimiento es probablemente el recurso intangible inmaterial más importante del que disponemos en los países occidentales civilizados

y en definitiva mejorar la vida de la humanidad el día tres de octubre señorías de manera inopinada y casi secretiva el gobierno vasco decidió unilateralmente suprimir las becas de excelencia

con esta iniciativa que trae hoy aquí mi fuerza política queremos reinstaurar

de excelencia queremos reparar una injusticia que el gobierno vasco cometió con jóvenes estudiantes brillantes estudiantes que se han visto defraudados en su itinerario

a unas becas de excelencia académica que se pusieron en marcha en dos mil diez como apuesta de fondo para avanzar en el conocimiento

de nuestro alumnado universitario jóvenes que ya estaban enrolados en este programa y a los que se había asegurado en la página web del departamento de educación que sus becas sería renovadas que estaban en proceso de tramitación

de la noche a la mañana señorías no obstante se les comunicó en esa misma página que esas becas prometidas se iban a suprimir por motivos económicos sin otra consideración sin otra explicación

lo cual nos enfrenta claramente a dos cuestiones dos cuestiones bien importantes ambas la primera la vulneración

por la incentivación del talento más allá incluso del nivel de renta que habíamos venido trayendo ya algunos años

el debido respeto a los administrados vayamos con la primera

publicada en el bopv el veintinueve de septiembre del dos mil diez con el objeto

sesenta becas de excelencia académica destinadas al alumnado de alto rendimiento matriculado en enseñanzas de grado o nivel académico

la finalidad no era otra sino la de potenciar la excelencia en el estudio y las tareas de investigación del alumnado universitario estas becas señorías a diferencia de las becas generales o de investigación no tienen en cuenta

el nivel de renta tienen que ver son becas competitivas subvencionales no son becas de derecho subjetivo

con el rendimiento del alumnado así los que compitieron por estas becas tenían una nota media tuvieron una nota media

y un nueve coma nueve salieron como les digo sesenta becas en esta primera convocatoria

euros sesenta becas cincuenta de ellas para estudiar

del sistema universitario vasco o situadas en el país vasco y con la modalidad de las otras diez becas

para poder estudiar grados que no

que no se proporcionaban en esta comunidad para poder estudiarlas fuera bien en el resto de españa o bien en el extranjero la convocatoria se resolvió con fecha de diciembre bopv de tres de febrero y conseguimos

un beneficio de la apertura de una línea de incentivación del talento de estímulo al alto rendimiento de distinción del trabajo por el conocimiento

y esto es lo que ha sido desconsiderado con lo cual entramos en la segunda cuestión la falta de respeto a los administrados el respeto debido a los administrados la indignación de los administrados porque realmente

que están implícitos en este programa pero varias cartas escritas al gobierno a los grupos parlamentarios han ido manifestando su irritación por lo que significa como dicen ellos el gobierno vasco suprimió el pasado tres de octubre definitivamente de manera silenciosa dichas becas que había puesto en marcha el gobierno lópez para

alegando problemas económicos lo más irónico es que otra esperanzadora nota había ocupado ese mismo lugar hasta el día anterior

y se preguntan a qué están jugando los políticos esos políticos que se vanaglorian ensalzando en cada discurso la excelencia del sistema educativo vasco que afirman apostar firmemente por la investigación y el desarrollo como única vía para salir de la crisis

tra tra tra es decir señorías realmente

que realmente están apostando por la investigación y el desarrollo y aquí desde luego no podemos mencionar de ninguna de las maneras al gobierno de españa por la voladura

al que le está recortando más de un cuarenta por ciento lo cual tendrá repercusión y tiene repercusión no solo en el presente y el inmediato futuro sino en el futuro de un país nosotros no podemos de ninguna de las maneras alinearnos con esa política somos un país pequeño

de ir más deprisa porque los demás se nos separan porque avanzan por tanto esta es una línea de identificación clarísima del talento necesitamos investigadores en esta comunidad necesitamos científicos en esta comunidad gentes que creen conocimiento para que podamos competir

a nuestro sistema de producción si lo necesitamos tenemos que seleccionarlos desde abajo tenemos que seleccionarlos de manera temprana señorías las becas de excelencia no tienen nada que ver con las becas generales

es decir en esta comunidad y afortunadamente son becas que cuando realmente se llega a un nivel de renta a un determinado umbral de renta y se tiene un cinco

no están conectadas con la renta ni deben estarlo son otra cosa son becas competitivas para incentivar el talento las personas también

desde un umbral de renta muy bajo a ser botín de apellido oiga hay una amplia gama las personas por ser personas tienen derecho a tener una vida y además a trabajarla por tanto nos estamos jugando la cuestión de fondo nos estamos jugando lo que es una apuesta inequívoca por el desarrollo del talento nos estamos jugando lo que significa la política que hemos venido siguiendo que hemos venido alumbrando desde el gobierno lópez y algunos otros antes pero desde luego con gran intensidad desde el gobierno lópez y así reconocido por muchas personas

jugando lo que significa esa apuesta inequívoca por el desarrollo del talento por la identificación del talento por sembrar

por reclutar por repatriar y por retener por tanto señorías es inequívoco no vale ni uno millón de euros uno millón de euros

el departamento o el gobierno en su conjunto en otras muchas cosas cuya necesidad cuya necesariedad es muchísimo más dudosa por eso hemos parece llegado a una

para reinstaurar esas becas de excelencia que si bien pueden salir con el resto junto a la convocatoria de las becas ordinarias

específicas son vamos a ellas señoría porque esto es verdaderamente hacer política real

tenemos que incentivar el talento el talento propio tratar de atraer el ajeno pero estas son dos cuestiones tremendamente conectadas porque ningún talento ajeno llegará jamás a un país en el que se cambien todas las apuestas

para seguir lo que significa la vía del conocimiento nada más y muchas gracias eskerrik asko

quería seguir hablando lo cierto es que básicamente ha dicho todo lo importante que había que decir en relación a este asunto aunque por otro lado

distintos grupos creo que más allá de la enmienda de transacción se mantienen algunas dudas y algunas divergencias en relación a si

de excelencia académica o si se está hablando de premios o si se está hablando de modificar la forma en la que estas becas se han venido dando

turno el resto de grupos marcará posición en relación a este asunto pero sí que es cierto que hay una transaccional firmada por

los principales partidos de la cámara efectivamente como se ha dicho a comienzos del mes de octubre apareció en la página web del departamento de educación una breve nota en la que se anuncia que este curso no se realizará convocatoria

sobre dicha convocatoria las becas de excelencia tal como ha señalado la señora celaá se crearon en el año dos mil diez para premiar a los alumnos con alto rendimiento

dependiendo del lugar donde estudiara el alumno

aunque sí se seguirían respetando aquellos alumnos que ya disfrutaban de ellas siempre que su rendimiento académico siguiera siendo notable de hecho en el mes de septiembre se anunciaba en la web del departamento que la convocatoria de las becas estaba en trámite

del país vasco sin embargo a principios de este mes de octubre el mensaje se cambió por un escueto

nota problemas económicos nos impiden definitivamente publicar la convocatoria de becas de excelencia académica por lo tanto otra vez

económicos otra vez los problemas económicos como excusa de este gobierno para no implementar en este caso medidas que son fundamentales en nuestra opinión para primar el esfuerzo para primar la excelencia académica en este caso nosotros consideramos que es un hecho muy grave que se supriman estas becas que premian el esfuerzo el rendimiento una labor bien hecha

del conocimiento y es muy grave también que el gobierno haya engañado durante varios meses a esos jóvenes que disfrutaban de la beca diciéndoles que iban a seguir disfrutándola

explicación y sin dar la cara ante los afectados que llevaban semanas esperando la convocatoria y de ahí nuestra iniciativa de ahí nuestra proposición no de ley en la que proponíamos que este parlamento exigiera al departamento que dote económicamente para el curso académico dos mil trece dos mil catorce las becas para premiar al alumnado de alto rendimiento y proceda a la inmediata convocatoria

del gobierno vasco esta decisión supone una forma

a los alumnos universitarios que mejores calificaciones académicas han venido sacando y sacan en nuestra opinión es una contradicción decir que se apoya la excelencia académica

decir que se apoya el talento y después quitar estos alicientes para aquellos que lo están demostrando cada curso con sus calificaciones con su esfuerzo con su dedicación y es muy grave que se supriman estas ayudas a los jóvenes que han demostrado que creen en el esfuerzo y también es muy grave como se ha producido

etcétera finalmente suprimiéndolas de forma definitiva para todos con una nota en la web estos jóvenes se han sentido engañados y estafados y posiblemente alguno de ellos pensará que para qué sirve tanto esfuerzo por lo tanto

a estos recortes en una materia en la que el gobierno no solo no debería recortar sino que incluso debería reforzar como decía al principio hay una enmienda transaccional firmada por eh bildu grupo socialista el grupo nacionalistas vascos

yo no sé si piensa lo mismo el partido nacionalista vasco que el partido socialista de euskadi

este programa de becas de excelencia académica o no yo no sé si el grupo nacionalistas vascos está hablando más bien de premios y de modificar lo que se ha hecho hasta ahora

con ello más bien pienso que no están de acuerdo ustedes en algunas cuestiones pero en todo caso han sido capaces de firmar esta transaccional

lo iremos viendo porque ya digo que me parece que hay opiniones divergentes en esta cuestión más allá de que haya

en todo caso esperamos que esta transaccional que ustedes han firmado sirva para reinstaurar el programa de becas de excelencia académica sirva para primar el esfuerzo el talento y la dedicación de tantos jóvenes que son capaces de sacar gracias a estas dedicaciones y esfuerzos notas académicas extraordinarias excelentes

bueno en principio nosotros estaríamos dispuestos a votar a favor de esta iniciativa porque al fin y al cabo creo que recoge lo que nosotros proponíamos en nuestra iniciativa original

jaunak dauka hitza muchas gracias señora presidenta señorías

y se pone en marcha con el objetivo de incentivar a los alumnos con

como se ha dicho ya se dotaban según ese programa que nace en el dos mil diez esas becas dentro de

dependiendo de diversos parámetros inicialmente y según los datos que aportaba el propio departamento

bien hemos vivido como se ha dicho meses de incertidumbre falta de información yo diría que incluso informaciones contradictorias

en la página web del propio departamento que llevó a los alumnos a generar efectivamente una serie de expectativas en relación con la continuidad

de los alumnos como se explica perfectamente bien en la justificación del grupo proponente efectivamente muchos alumnos se habían hecho ya acreedores de dichas becas se había

con lo cual la supresión de ese programa produce un daño y además nos parece que genera

es el gobierno el departamento de educación quien decide suprimir el programa de becas como se ha dicho

breve anuncio con la única explicación de que se trataba

estrictamente por motivos económicos motivada estrictamente por cuestiones de carácter económico bien nosotros

desde el partido popular defendemos creemos

hablar no solo de equidad que es algo de lo que hablamos siempre y que especialmente tiene que ver con los programas generales

si queremos mirar al futuro de excelencia hablar

recurrente en todos los discursos de la comunidad educativa en los últimos años la apuesta por la excelencia

es algo en lo que creemos porque creemos que premiar el esfuerzo incentivar el talento tratar de que efectivamente

se pueda apoyar ayudar y premiar el rendimiento y el aprovechamiento de los mejores es algo

para retener aquí ese talento y para generar además valor añadido necesitamos incentivar a los mejores y por eso son necesarios estos programas de excelencia y desde luego además creo que se ha dicho aquí se ha explicado perfectamente qué se trata

exactamente las necesidades desde luego nosotros pensamos que no se pueden hacer de cualquier manera vamos a votar a favor de la transacción presentada por el grupo proponente y el grupo nacionalistas vascos por varios grupos de la cámara la vamos a respaldar en la confianza de que efectivamente

esos programas de excelencia pensamos que no se pueden hacer de cualquier manera seguimos creyendo que fundamentalmente

tienen que separarse de alguna manera singularizarse dentro del marco general del régimen general de becas que tienen

fundamentadas en los criterios de renta

el grueso fundamental del esfuerzo económico pensando además en esas becas que tienen que tener esa base social ese objetivo social

decisivo e importante necesariamente creemos que los programas

que tener un tratamiento singular específico no sé si lo mencionaba así la proponente isabel celaá tienen que tener un tratamiento específico dado que estamos en el momento en el que nos encontramos en octubre y que hay un compromiso en esa propuesta de transacción

se pueda dar respuesta a ese programa de excelencia dentro de este ejercicio creemos que se debe hacer de manera singularizada

no se desnaturalice lo que tiene que ser un programa de excelencia en el que no se tiene que valorar la renta sino que se tiene que valorar el talento el esfuerzo y el rendimiento de los alumnos

es preciso saber está la consejera aquí que tenemos el compromiso del gobierno de arbitrar los mecanismos necesarios

dentro del presente ejercicio para dar respuesta a aquellos alumnos cuya expectativa generada ya contaban con ello eso es lo que

a la iniciativa tenemos que pensar que si no otros nos cogerán la delantera este era un programa que

en los programas de excelencia todos los países la comunidad de madrid dedica a las becas de excelencia en la universidad

dos mil doscientos cincuenta alumnos de madrid se ha visto beneficiados

en la comunidad de madrid es una proporción que multiplica por siete el esfuerzo de nuestra comunidad

a las becas de excelencia de ciento ochenta y cinco alumnos beneficiados aquí la comunidad de madrid beneficia a dos mil doscientos cincuenta alumnos es decir si no hacemos un esfuerzo aquí

nos van a tomar la delantera claramente van a tratar de conseguir que allí estén los mejores y las personas más capacidades

los estudios superiores creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo creo que ha sido una apuesta clara

de todos los agentes del sector educativo y yo creo que también esto ha sido parte del discurso de los últimos años del propio partido nacionalista vasco creo que tiene que hacer un compromiso claro y firme en relación con esos programas y creo que hay otros sitios de donde quitar

la apuesta de este gobierno por esos programas de excelencia en educación muchas gracias eskerrik asko oyarzabal

eta beste bi milioi eta berrehun financiación de resoluciones de concesión que se adopten durante el ejercicio dos mil trece

laguntza orokorreko bekatan konponente ezberdinak dira importe de precios públicos material didáctico salario salario bera ere

señor etxeberria yo creo que para hacer política interesa mucho

fuerza para creer en lo que se dice es decir yo creo que la pasión precisamente es lo que podría diferenciar una tarea política de una tarea

de laboratorio administrativa en fin se lo digo esto por que también citaba al antiguo régimen antiguo régimen nuevo régimen contemporaneidad en definitiva

en ningún momento ejerciendo la labor en mi departamento de educación en la necesidad

en ningún momento es más estas becas datan de dos mil diez y todavía no le conocíamos pero yo les digo para no mezclar una cosa con la otra porque automáticamente señorías en cuanto parece que esta cuestión no toca la renta automáticamente se está pensado

pero ciertamente no estamos hablando de eso entre las cartas que ustedes señorías seguro han recibido hay muchas en las que dice tengo una nota media de más de nueve

y colaborando como monitor en la universidad sencillamente creo que me hago acreedor como he venido siendo a esa beca de excelencia pero señorías les digo más en un país como el nuestro en la que hay instituciones

premian incluso el vía crucis de balmaseda esto también se premia además de muchos premios que damos además de tener una política subvencional generosa que la tenemos

resultados de redacción trabajos de ciencia trabajos

de política exterior curiosamente no sé por qué se suscitan dudas cuando se quiere incentivar una línea de talento punto sin consideración de la renta no lo puedo entender no se puede entender y nada tiene que ver señor agirrezabala

este hecho con el asunto de que efectivamente el treinta por ciento en francia son becas mientras que aquí estamos a un nivel de dieciocho por ciento con que tengamos unas becas de excelencia que abren una línea para incentivar el talento punto

todo lo que sea necesario en esas que son derecho y por eso nos hemos distanciado de la política del gobierno de españa de la administración general del estado porque queremos crecer y mejorar esas becas que realmente apuestan por la equidad nada que ver

también abramos una línea de incentivación del talento por qué porque eso abre futuro para la comunidad abre futuro les llamamos becas de excelencia y creo que hemos firmado salvo que ustedes señorías ahora quieran romper el acuerdo claro si hemos firmado

el parlamento vasco insta al departamento de educación política lingüística y cultura consejera a reinstaurar el programa de becas por excelencia académica

para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto rendimiento introduciendo dichas becas de excelencia como un apartado específico en la normativa ordinaria de becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores dentro del presente ejercicio

convocatoria de becas está en la calle para el dos mil trece dos mil catorce habrá que arbitrar los mecanismos necesarios para que las becas de excelencia aparezcan como un apartado específico como específicas son

el alto rendimiento del alumnado punto sin consideración de su renta para las rentas tenemos otras vías que son las generalistas en las que

tanto como para no tener en cuenta que aquellos alumnos que no tienen recursos económicos han de verse privados del acceso a la universidad si no sacan una nota alta que es precisamente la política de wert por tanto

en nota para acceder a la universidad y a los bienes de este mundo son las que deben ser consideradas en exclusiva

estas son distintas estas incentivan el talento y yo creo que el gobierno vasco será sensible y entiende perfectamente
lo que estamos haciendo muchas gracias eskerrik asko celaá andrea

ez dakit si lo voy a expresar con toda la pasión que usted quiere o no pero le aseguro que

las dos cuestiones que anteriormente le hemos dicho reinstauración del programa de becas

en la convocatoria de becas de ayudas generales eso es lo que nosotros hemos firmado y es lo que aparece aquí es lo que nosotros hemos defendido y lo que he intentado defender en mi primera intervención por lo tanto

estamos de acuerdo yo creo que hemos hecho un ejercicio importante y que todos seguimos de acuerdo sí le digo señora celaá

legebiltzarburu andrea creer en lo que se dice la pasión la templanza

trabajar las cosas con templanza pasión y templanza porque muchas veces la pasión de defender aquello que hemos puesto en marcha nos hace perder la templanza

puedo ver pasión por defender lo del trabajo que se ha podido realizar

y sobre todo a trabajar con la cabeza y a defender aquello que creemos

por la labor de la equidad pero yo creo que todos los demás sí ha leído usted una carta en la que

un alumno reivindicaba su esfuerzo hay mucha gente que hace un esfuerzo y no para llegar a un nueve o un diez

gente en muy malas condiciones socioeconómicas

de valorar la excelencia no tanto el esfuerzo y si queremos valorar la excedencia y realmente queremos tener alumnos excelentes creo

pero yo creo que realmente les ayudaremos si tenemos un buen sistema universitario y ahí es donde nuestro

mejorando el sistema universitario haciendo que las tasas de éxitos sean mejora haciendo que las notas sean mejores

entonces yo creo que usted misma nos decía que nos mezclemos las cosas

tiene o que no debería tener porque no porque no son becas y la misma oficina de control económico se lo dijo que no eran becas

pero queda bien becas de acuerdo entonces hemos llegado a un acuerdo

en la reunión que hemos tenido previa a la firma le hemos explicado cómo lo entendíamos

eh bildu y el grupo nacionalista vasco en el que insistíamos en que la becas de excelencia o

ámbito socioeconómico dentro de las becas normales y usted

entonces espero que cuando vayamos a negociar los siguientes presupuestos si usted ha sido capaz de firmar esto

eguerdi on alguien pensaba que no nos atreveríamos

teoría de parvulario que se formuló como todo es eta

el caso bateragune se organizó una operación policial contra personas que celebraban una reunión en el ejercicio de sus derechos políticos más fundamentales

con contenidos pacíficos con objetivos aún más pacíficos el sumario se construyó sobre una acusación predeterminada que se sostenía no ya en ausencia de pruebas sino más sorprendente aún ausencia absoluta de hechos delictivos una acusación etérea indeterminada que no aportaba ni un solo elemento ni un solo indicio del que se pudiera establecer una conexión entre estas personas y la organización eta la vista oral fue un auténtico despropósito

sendo bat izan dena la propia sentencia de la audiencia nacional reconoce

una nueva estrategia cierto realizaban labores de coordinación impulso

cierto llevaban una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas cierto

una portavocía autorizada cierto pero la sentencia de la audiencia nacional erraba en la conclusión

ni bajo las ordenes ni en conexión ni en colaboración ni en pertenencia ni integrados en eta lo hicieron desde su propia convicción y con su propia resolución tal vez el argumento más clarificador de la sentencia condenatoria que indica hasta qué punto estaba errada es el que asegura que

se pretendía primar la faceta política sobre la militar sin abandonar esta última hecho que la realidad ha rebatido contundentemente

utilicen medios violentos e intimidatorios destinados a imponer sus tesis radicales no podían estar más equivocados

que se hizo pública tan solo un mes después de dictarse esta sentencia

la propia sentencia y la credibilidad de la audiencia nacional

especulaba no instituía verdades hacía conjeturas conjeturas que además eran erradas como se pudo determinar poco después

y qué no es eta la ciudadanía lo hace con claridad en el proceso de paz abierto en torno a lo que después se conocería como las conversaciones de loyola

la política y la técnica quienes siguieron ese proceso podían ver con claridad la dicotomía de agentes lo que cada cual representaba los papeles que

algo que después también tuvo reflejo asimismo en la declaración de aiete que interpelaba por un lado a eta y los gobiernos para que trabajen en la distensión

violentas del conflicto y llamado por otro a actores no violentos y representantes políticos para que se reúnan y discutan cuestiones políticas

la ciudadanía lo hace con claridad es por eso que es más llamativo aún un tribunal especializado en ello un tribunal excepcionalmente configurado excepcionalmente designado para realizar ese trabajo

todas las fuerzas políticas reconocían que hb era un interlocutor importante y diferenciado respecto a eta

jueces que presuntamente deben establecer fehacientemente hechos que transgreden bienes jurídicos protegidos por las normas penales

política genuina transparente y un hecho delictivo por integración

o tal vez no sea una mera cuestión de dioptrías sino

haya detrás una motivación política para que esto sea así haya detrás un interés perverso ya sea represivo ya sea de venganza política

procesos políticos abiertos en cualquier caso interés

jurídico que es el que precisamente les otorga la audiencia nacional horrelako interpretazio interesatuekin eta horrelako ondorio

gracias presidenta buenos días vamos a desmontar las falacias del señor

vamos a desmontar las falacias y las mentiras de los servicios auxiliares de eta se dice en la justificación de la iniciativa presentada por ehb que a partir de mil novecientos noventa y ocho se generalizó en los tribunales españoles la dinámica

política o social falso fueron numerosos los procesos penales abiertos basándose en la teoría de que todo es eta falso

nosotros no somos eta los partidos políticos democráticos no son eta el gobierno no es eta la sociedad democrática

las víctimas del terrorismo no son eta todos los que han sufrido el embate del terrorismo

han impulsado también desde cada uno sus posiciones

eta como banda terrorista y unos servicios auxiliares que durante décadas han prestado servicio a eta y han justificado

se dice en esta iniciativa que se han clausurado partidos políticos asociaciones o medios de comunicación cientos de personas han sido detenidas encarceladas preventivamente

falso también falso también ustedes conocen perfectamente la historia que evidentemente quieren manipular de hecho ustedes han sido protagonistas de esa historia ustedes han sido

de esa historia que hemos sufrido los ciudadanos vascos se lo explico aunque ustedes la conocen perfectamente bien ustedes evidentemente quieren manipular la historia pero la historia es la que ha sido en euskadi y la que hemos conocido y la que sabemos que ha sido ha existido una

que lo que ha hecho ha sido secuestrar extorsionar amenazar y asesinar y ha habido unos servicios auxiliares de eta que han justificado

este es el resumen de la historia una banda terrorista que ha intentado con la democracia provocar víctimas inocentes e imponer su proyecto político totalitario y luego están ustedes que son los servicios auxiliares de eta

permitir que eta haya existido durante décadas

ha existido en euskadi por lo tanto no traten de engañar a la ciudadanía no traten de manipular la historia porque la historia no se puede cambiar y es la que es y ustedes efectivamente han sido actores principales ustedes han sido los que han

el terrorismo a través de intentos de justificación de lo injustificable eso es lo que ha ocurrido esa estrategia que habitualmente el señor

denomina como la estrategia político militar de la izquierda

unos asesinan unos han asesinado y otros han pretendido explicar o justificar

esos asesinatos esa es la historia de euskadi de los últimos treinta años una banda terrorista y unos servicios auxiliares para ayudar a esa banda terrorista para ayudar a sostener a esa banda terrorista para hacer que esa banda terrorista se mantenga en el tiempo y a día de hoy todavía siga viva

para imponer su proyecto político totalitario y un estado de derecho

defenderse defenderse de eta y de los servicios auxiliares de eta

que ha impulsado la colaboración con francia que ha impulsado la lucha policial y judicial que aprobó en su momento la ley de partidos y que ha venido deteniendo

a eta y los servicios auxiliares de eta y por otro lado tenemos el estado de derecho que ha tratado de defender la democracia esta es la realidad de los hechos es ciertamente curioso que en la justificación se diga que arnaldo otegi rafa díez

hayan sido acusados de ser miembro de grupo armado y a continuación se diga que sin embargo

para poder cambiar radicalmente los parámetros del fuerte conflicto existente hasta entonces es decir ustedes llaman conflicto político a los asesinatos de eta es decir a la lucha entre la democracia y

eso es la idea o el propósito por parte de eta con su ayuda de imponer un proyecto político totalitario

condenatoria y que se impuso una serie de penas a estas personas en nuestra opinión teniendo en cuenta la trayectoria de estas personas nos parece de justicia que a día de hoy estén donde se encuentran es curioso también los servicios auxiliares de eta hablen en su justificación de juicio justo y de garantías es ciertamente curioso que en su justificación de la iniciativa hablen de juicio justo y de garantías los defensores del tiro en la nuca los defensores de la pena de muerte sin ningún tipo de garantías

entre comillas durante años los asesinatos de eta y las vulneraciones de derechos humanos por parte de la banda terrorista eta los que siguen sin condenar a eta es decir ustedes

o a presos de eta es ciertamente curioso que ustedes hablen de juicio justo y de garantías cuando nunca han respetado los más básicos principios de la democracia y se dice finalmente en la justificación que el tiempo ha probado díez zabaleta jacinto y rodríguez estaban trabajando a favor de la paz y de la normalización

ni ustedes han trabajado jamás a favor de la paz y de la normalización

las acciones criminales de una banda terrorista llamada eta ese es su pasado esa es la historia y esa es la realidad de los hechos y es conveniente que también

a recordárselo a recordarles cuál es su trayectoria cuál es su trayectoria de amistad de unión con los terroristas de eta alguien se lo tiene que decir y se lo digo yo desde

ustedes quieren manipularla quieren pretender engañarnos pero no la hemos vivido hemos vivido aquí durante años hemos vivido aquí durante toda nuestra vida sabemos qué es lo que ha habido

a esas personas algunas de las cuales se citan aquí que durante décadas han venido justificando lo injustificable y en concreto vulneraciones de derechos humanos

mujeres y niños esto es lo que han hecho los servicios auxiliares de eta durante décadas justificar lo injustificable

cinco procesados porque están bien donde están y porque nosotros defendemos la justicia y ustedes defienden la impunidad y nosotros no defendemos la impunidad nosotros defendemos la justicia ustedes quieren que todos los presos salgan a la calle nosotros no nosotros queremos que se haga justicia nosotros queremos que se cumplan

ustedes defienden por lo tanto a los delincuentes nosotros defendemos a las víctimas del terrorismo nosotros defendemos el estado de derecho nosotros defendemos a la sociedad democrática ustedes defienden a los delincuentes nosotros no nosotros defendemos

nosotros defendemos a las víctimas del terrorismo y además no vamos a cejar en nuestro empeño nosotros vamos a seguir exigiendo a la fiscalía y ayer mismo lo hicimos vamos a seguir exigiendo a la fiscalía que actúe

organizaciones que han enaltecido están enalteciendo

a los presos a los criminales de eta esa es la posición es la historia por lo tanto ustedes defienden a los delincuentes nosotros defendemos la democracia la sociedad democrática la dignidad de la sociedad vasca eso es lo que nosotros defendemos y por lo tanto votaremos obviamente en contra

de este disparate que ustedes han traído a la sesión de hoy gracias eskerrik asko maneiro jauna

señora presidenta egun on guztioi voy a comenzar con una apelación que en esta cámara se hace muy a menudo y es esa apelación que se hace al futuro pero para mirar al futuro

hay que hacerlo desde la verdad del pasado y desde la realidad del presente y en la proposición y hoy aquí en su intervención aun más utilizan conceptos

ni con la realidad del presente y dan de una forma totalmente interesada una imagen absolutamente absolutamente distorsionada de ambos

y voy a empezar por algo que nuestro grupo considera una obviedad y que a tenor de lo puesto de manifiesto por usted

para ustedes ni ha sido obvio nunca y sigue sin serlo españa es un estado social y democrático de derecho y como tal

y se sustenta en el principio de separación de poderes que establece un sistema de autocontroles y contrapesos para evitar ejercicios desmesurados y abusivos de nuestro ordenamiento jurídico

afortunadamente disfrutamos de un sistema legal plenamente garantista articulado en mecanismos que garantizan un ejercicio equilibrado moderado y ponderado del poder

de juicios por pertenencia política los derechos y libertades fundamentales que se aplican al conjunto de la ciudadanía se hacen sin excepciones al margen de pertenencias de militancias de afiliaciones o de simple afinidades ideológicas afortunadamente el derecho en nuestro país disfruta de un rango supremo y todos

ese derecho penal del enemigo al que usted ha hecho referencia

su consecuencia la pena solo puede ser aplicada por los tribunales de justicia y solo por los tribunales de justicia y las afirmaciones y alegaciones que usted ha hecho hoy aquí podrían y seguro que han sido establecidas y pedidas por los abogados de la defensa pero desde luego aquí no tienen cabida en españa todos los procesados mantienen intactos entre otros muchos su derecho a la defensa el derecho a un tribunal imparcial su derecho a prestar testimonio durante la fase oral el derecho a la utilización de las pruebas periciales

derechos que no tuvieron muchos que fueron vulnerados sistemáticamente por algunos a quienes ustedes siguen a día de hoy sin condenar

de esas posturas parciales que usted dice del tribunal y que reza la iniciativa en el caso de que nos ocupa por parte de la defensa se presentaron hasta cincuenta y tres testimonios que fueron admitidos y todos

de cortapisa por parte de los miembros del tribunal porque esa es la verdadera encarnación de la democracia y de nuestro estado de derecho señor arzuaga que todas las personas acusadas por delitos

no por pertenencia política no por terrorismo conservan impolutas todas sus garantías constitucionales y en ese sistema de garantías y libertades fue como usted ha dicho un recurso el que rebajo la pena

por considerarle integrante y no dirigente de la banda terrorista pero también cabe recordar que durante la fase oral del juicio el señor otegi al que algunos ahora pretenden presentarnos como el nuevo

como si del euskogandhi del siglo veintiuno se tratara se negó a condenar la actividad criminal de eta

jamás han condenado la actividad criminal de eta y eso no puede pasar inadvertido más aún el señor otegi para justificar la reconstrucción de bateragune utilizó expresiones como

un cambio de estrategia usted mismo lo ha dicho

tratando en todo momento de omitir mediante eufemismos que no es sino una banda terrorista

la participación política constituye un derecho sí fundamental y consagrado en nuestra constitución pero tiene que ser eso participación política y no esconder otra cosa

tiene que articular mecanismos que traten de proteger ese derecho y que traten de evitar actitudes que revestidas de participación lo que pretenden es un fraude político al sistema la democracia se tiene que blindar frente a quienes en un ejercicio de transformismo político lo que pretenden es aprovechar el entramado institucional para y boicotearlo no podemos permanecer impasible

carnaval para esconder un fraude político y quienes creamos en la democracia y en las garantías del sistema tenemos la obligación de desenmascarar a los defraudadores y hacerlo

la que ha vencido a eta a la banda terrorista la han derrotado la sociedad democrática la ley la justicia y la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado cuya acción hoy aquí

que ha conseguido desmantelar muchos comandos y que

para conseguir pruebas concluyentes que encausar y posteriormente condenar a los delincuentes y muchas de las pruebas aportadas en el caso de bateragune tuvieron origen en la documentación incautada en el año dos mil ocho al comando de eta hego haizea

los referentes internacionales últimamente se entregó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado

que tenía como misión la ejecución de los planes estratégicos previamente trazados

no es solamente las acciones violentas eta constituye un proyecto de ruptura que presenta distintas esferas de actuación es un ente consorciado donde cada uno de sus eslabones

para la ruptura de nuestro sistema democrático en eta hay un claro reparto de papeles los comandos son los actores principales sí pero alrededor de él trabajan un montón de actores secundarios y de extras los comandos son

pero para su sostenimiento y la justificación de sus acciones necesitan de ese complejo societario contra los que algunos pretenden decir ahora

eso no es cierto eta necesitaba de un aparato para internacionalizar el mal llamado conflicto un aparato de financiación que le nutriese de recursos económicos un aparato para mantener la ortodoxia entre el colectivo de ex presos y explotar su victimismo y un brazo político que actuase como altavoz

que usted hoy aquí ha vuelto a reiterar por tanto eta es un proyecto de ruptura

una división absolutamente marcada y delimitada y todo ello recogida en el vademecum estratégico criminal

hoy más que nunca queremos poner en valor la ley de partidos

y ha sido refrendada en varias ocasiones por las instancias judiciales europeas como le decía antes eta ha sido derrotada por el estado de derecho y el cese de la actividad armada esa nueva estrategia según usted

sino que ha sido una decisión que se sustenta en planteamientos provocados por su derrota frente a los poderes del estado

dosis de sufrimiento pero no para conseguir ninguno de sus objetivos hoy que ustedes parecen haber descubierto al tribunal de derechos

ha sido el que dictó las sentencias sobre ilegalizaciones de herri batasuna euskal herritarrok batasuna y la más reciente anv y este tribunal el que se expresaba sobre estas ilegalizaciones diciendo

la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos indicaba que no había habido violación de la convención europea de derechos humanos relativa a la libertad de reunión y asociación y expresó que la ley de partidos no estaba destinada a prohibir la defensa de idea o doctrinas

constitucional sino a concitar la libertad y el pluralismo con respecto a los derechos humanos y la protección de la democracia todo esto lo decía ese tribunal al que parece que ustedes acaban de descubrir y decía también que la ilegalización era una necesidad social por tanto las instancias europeas esas que ustedes ahora apelan

orquesta con un director y un buen número de músicos cada uno con su propio instrumental pero que forma un todo que tocan

voy terminando ya somos perfectamente conscientes de que su objetivo y el de algún otro es instaurar esa teoría del empate infinito tratando muchas

una idea rotundamente falsa una imagen simétrica entre eta y los poderes del estado en materia de vulneraciones sufrimientos y responsabilidades y desde aquí les tenemos que decir alto y claro que este grupo parlamentario no va a asumir su relato

ni como epílogo porque su narrativa cuando es leída

en la democracia y muy especialmente para las víctimas del terrorismo no vamos a dar por bueno

no vamos a aceptar lecciones de moralidad ni vamos a aceptar reproches éticos por quienes se han jactado alimentado y nutrido del sufrimiento ajeno a aceptar planteamientos que no conllevan al reconocimiento del daño causado no y no vamos a transigir con aquellos que a día de hoy pretenden sustituir el arrano beltza y la serpiente a la paloma

gracias señora presidenta señorías yo comenzaré recordando y recordándole especialmente a su grupo y a usted

en un estado de derecho donde los tribunales de justicia actúan con independencia y las decisiones que adoptan los tribunales son recurribles a instancias superiores como es este caso que nos ocupa

pensamos que no tenemos ninguna facultad como parlamento para inmiscuirnos en las decisiones adoptadas por los tribunales de justicia como usted nos propone

simplemente que este parlamento se convierta en una especie de tribunal de última instancia para revisar sentencias judiciales incluso he querido entenderle para disolver tribunales y esta no es nuestra función usted

nosotros pensamos que no hay ninguna razón para suspender las causas penales contra las personas que han sido enjuiciadas

sino por formar parte de eta o por tratar de dar continuidad a organizaciones

no lo digo yo lo dicen los tribunales una ley por cierto que su aplicación fue avalada por el tribunal de derechos humanos de estrasburgo el mismo tribunal que tanto aplauden ustedes ahora

sí este tribunal avaló la aplicación de la ley de partidos incluida la ilegalización de batasuna y sus marcas

hemos defendido entonces que había que respetar y acatar esa decisión

también defendemos ahora que hay que acatar y cumplir la sentencia

por mucho dolor y sufrimiento que provoque en las víctimas y que nosotros compartimos pero vivimos en un estado de derecho en el que

y cumplir las decisiones de los tribunales el problema es que el pse acata todas las decisiones de los tribunales y ustedes desgraciadamente

que les dan la razón yo puedo reconocerles que con una sentencia de seis años y parte de la misma cumplida

y ustedes no vienen a este parlamento para hablar de esta cuestión sino que vienen para hablar de otras cosas como he dicho usted dice en su justificación de la iniciativa

se estaban produciendo movimientos de fondo en el escenario político para poder cambiar radicalmente los parámetros fruto del conflicto existente hasta entonces

de aquellos cambios usted con esta afirmación viene a reconocer lo que todos sabíamos defendíamos y decíamos que antes de esa época el mundo de batasuna

amparaban justificaban y daban cobertura a la violencia terrorista

por lo tanto no traten de confundirnos quienes fueron detenidos el trece de octubre de dos mil nueve sabían perfectamente que esa posibilidad

y no vengan ahora con historias victimistas de persecuciones simplemente lo hacen porque quieren justificar una trayectoria de apoyo a la violencia

por una determinada militancia política y social como usted propone en su escrito sino que se han abierto procesos contra personas por desarrollar actividades

una supuesta presunta sistemática persecución

contra representantes de sectores políticos de la sociedad vasca que arrancaría a partir del año mil novecientos noventa y nueve mire yo en nombre de mi grupo les pido pudor y respeto a las víctimas porque recordamos muy bien ese periodo tenemos muy claro en la memoria quiénes nos perseguían recordamos muy bien

a fernando buesa a tantas personas que la organización terrorista asesinó y recordamos también que cuando esto ocurría los diligentes de batasuna callaban cuando no jaleaban o amparaban estos asesinatos y las acciones de eta recordamos muy bien quiénes quemaban casas del pueblo quiénes intimidaban a los ciudadanos

y también recordamos muy bien que los dirigentes y militantes de batasuna callaban o justificaban estas acciones porque participaban en la estrategia de la banda terrorista eta recordamos muy bien

y el sufrimiento recordamos muy bien quiénes la defendieron y quiénes la impulsaron recordamos muy bien

y quiénes colaboraban con esos autores recordamos muy bien cómo

la guardia civil la policía nacional jueces periodistas sufrían amenazas y muchos fueron asesinados simplemente por cumplir con su deber

que luego el mundo de batasuna evolucionó y en esa evolución positiva hacía la democracia

lucía etxebarri y otros tuvieron un papel destacado y nosotros celebramos esa evolución

para que desarrollen su actividad política respetando plenamente los derechos humanos

que es necesario construir el futuro juntos pero hay que hacerlo sobre memoria verdad y justicia sobre principios éticos y democráticos básicos por eso no vamos a admitir que pretendan cambiar la historia de lo que en este país

y el daño que hemos tenido que sufrir a causa de las actividades terroristas una historia de horror y de complicidad suya sí suya con eta

justificar pero que en todo caso supuso

de nuestra historia no quieran hacer creer que los años de plomo del terrorismo etarra ustedes pasaban por allí porque nadie se lo cree

cuando afirmaba desde la cárcel no ha sido el pueblo vasco

sino que hemos sido nosotros quienes hemos acabado de conectar

por o para sustituir la estrategia anterior

democráticos la apuesta actual se puede decir más claro pero en todo caso es evidente que lo que ustedes hacían

por apoyar y amparar el terrorismo y cuando recientemente han apostado por la confrontación en términos democráticos lo que dicen es que ahora apuestan por respetar las reglas del juego y la legalidad

nos alegramos por supuesto de que eta se haya visto obligada a abandonar la acción terrorista por la presión del estado de derecho y que ustedes

la ley de partidos pero lo que en ningún caso vamos a permitir es que ustedes pretendan rescribir la historia y justificar

estamos dispuestos a que con el fin del terrorismo podamos por fin avanzar en resolver muchos de los problemas que tenemos como sociedad

estamos absolutamente convencidos que en ese camino es imprescindible para hacerlo sobre bases sólidas respetar el ordenamiento jurídico respetar la separación de poderes

y también cómo no reclamamos a los jueces que tengan en cuenta la realidad social

una política penitenciaria más dinámica y flexible que tenga en cuenta la situación en la que nos encontramos que facilite con más rapidez el recorrido de los presos y así

nosotros defendemos el derecho de los presos a la reinserción

ustedes no ustedes simplemente no quieren reinserción ustedes quieren abrir las puertas de las cárceles y esto no es lo que se puede hacer en un estado de derecho ustedes

inviables que saben que generan frustración en una gran parte de ellos porque no entienden se lo he dicho en otras ocasiones que ustedes puedan acogerse a la legalidad

sin ser tachados de traidores a las medidas penitenciarias que les lleve lo antes posible

yo les emplazo a que tenga la valentía de cambiar también aquí de que animen a los presos a que puedan acogerse a las medidas y recorridos individuales previstas en nuestra legislación porque seguramente también ese camino resolverá muchos de los problemas que hoy tenemos pendientes

a hacer política respetando las reglas de juego los derechos humanos

hemos conquistado por fin definitivamente el fin del terrorismo ahora nos queda conseguir que eta desaparezca definitivamente pero tenemos que conseguir también asentar

lo más importante es hacerlo respetando las reglas de juego democráticas respetando el estado de derecho

delituak leporatzeko sustentando el terrorismo ayudar

no se puede tolerar no se puede tolerar que se profieran calumnias que se perpetre el delito de calumnias desde este

de los parlamentarios señor maneiro le diría a usted que si tiene

vaya a los tribunales lo que pasa es que me da pavor hacerle esta recomendación porque sé cómo actúan tribunales y eso es precisamente eso es precisamente el elemento el contenido que hoy traemos a esta cámara se hace una

a la virtud del estado de derecho un estado de derecho que presuntamente avala la separación de poderes precisamente en las palabras de aznar era donde traía yo que no hay una libertad de poderes inmediatamente se mezclan las atribuciones del ejecutivo con las atribuciones judicial recientemente fernández díaz nos da la explicación de por qué se habían producido las detenciones de personas de herrira

criminalizar a él le compete castigar esos delitos se habla

imparcial y nos encontramos con una pléyade de tribunales de excepción

a la ruina simplemente excepcionemos la ley y eso es precisamente lo que se ha hecho en el estado español buscar nuevas medidas de excepción

interpretadas por dioptrías de excepción en tribunales de excepción

una metáfora era de las palabras parece que la única palabra que se puede pronunciar cuando se hablan de estos temas es

expresarse de otra manera interpretar lo que ha sucedido estos años aportar soluciones con otra terminología qué es un hecho delictivo qué es una prueba de cargo el silencio es una autoincriminación

es ser un actor secundario de no sé qué estrategias de no sé que tipo reunirse manifestarse expresarse manifestarse

es pertenecer a un holding señor ares nos dice que en este estado de derecho se pueden recurrir sentencias irregulares

que no se den sentencias irregulares que después se tengan que recurrir hasta llegar incluso a tribunales a tribunales

los jueces naturales los que puedan intervenir en esos casos usted nos hace un alegato de victimización pero también calla

la existencia de otras víctimas que no aparecían en su listado realiza usted un relato parcial qué quiere quehaga que le vincule yo a usted a otras violencias

porque prefiero quedarme con una opinión que el propio pse dijo

que se aplique el principio de realidad social porque esta ha cambiado desde la detención

y esas palabras son las que yo considero que son las adecuadas y las que considero que nos acompañan y que nos ayudan a salir

cuatro años de cumplimiento de pena por hablar por expresarse por manifestarse por reunirse no son de recibo

recientemente adoptada con la doctrina parot yo creo que nos llama a una reflexión

y un castigo de prisión en justicia cómo se verifica la adecuación entre los hechos constitutivos de delito

para tenerlos cuatro años en prisión sin posibilidad de atenuar sin posibilidad de acortar para nada ese periodo

a la resocialización de la persona presa en el caso que nos ocupa cuál es proceso de resocialización al cual se debería plegar

cuál es coincide los cuatro años de prisión con otros años de prisión que han sido también cumplidos

otros personajes tales como rodríguez galindo julen elgorriaga o

perpetradores de horribles hechos de terrorismo de estado y condenados a decenas de años cuatro años de cumplimiento me hablarán ustedes de estado de derecho

de igualdad ante la ley eskerrik asko arzuaga jauna mistoa

gracias presidenta señora arzuaga

las suyas permanentemente llevamos diez meses soportando calumnias mentiras manipulaciones y el cinismo pleno tras pleno

de eh bildu o de los servicios auxiliares de eta llámense ustedes como

y cuando ustedes traen a esta cámara estos debates y plantean la impunidad de algunos delincuentes

es ez daukazu hitzik que haya quien baje a esta tribuna a decir

tal como ha ocurrido hoy por lo tanto nosotros no vamos a admitir las mentiras habituales de los servicios auxiliares
mentiras manipulación y cinismo el resumen es sencillo

pretende presentarse como víctimas algo que se repite permanentemente en los últimos tiempos los que han sustentado a eta quieren presentarse

ustedes no pasaban por allí ustedes han venido acompañando a eta los que acompañaron a eta los que justificaron los que sustentaron a eta los cómplices de eta los amigos de eta los servicios auxiliares de eta se lo han dicho ustedes no pasaban por allí sino que apoyaban apoyaron y apoyan a eta

siguen sin pedir a eta que desaparezca siguen sin condenar a eta

la impunidad de delincuentes a defender también la historia criminal

nosotros no vamos a pertenecer a ninguna mayoría

uso de la palabra y se lo vamos a decir a la cara pleno

la verdad de los hechos ante su pretensión de manipular la historia

en fin señor egibar usted ha leído la justificación de esta iniciativa usted

yo creo que si el partido nacionalista vasco en el día de hoy vota esto que nos ha presentado eh bildu es decir los servicios auxiliares de eta está justificando o está

las mentiras de la izquierda abertzale y las manipulaciones históricas y esto

nos parece absolutamente grave estarían defendiendo la impunidad y estarían defendiendo la manipulación de la historia por lo tanto

ciertamente grave que usted no lea atentamente lo que dice esa justificación y las mentiras reiteradas de eh bildu ustedes tienen que decir también que no ustedes tienen que unirse

que venga aquí un grupo político que sigue justificando a eta sin condenar a eta que sigue sin pedir a eta su disolución incondicional que haga

esta iniciativa yo les pregunto nuevamente si han leído la justificación y si están de acuerdo

grave si votan a favor votarán a favor de las mentiras

votarán a favor de la manipulación de la historia y votarán a favor de la impunidad

cuatro somos partidos políticos democráticos uno no lo es uno

que se disuelva no ha exigido su disolución definitiva e incondicional el resto somos demócratas usted tiene que unirse de demócratas para no permitir que este parlamento pida la excarcelación de unos delincuentes usted decía que ha escuchado discursos duros y en fin venía a intentar recordarnos que eta ya no existe bueno eta todavía existe y no se ha disuelto en todo caso

todos los días manipular la historia y nosotros no podemos permitir que la manipulación de la historia que pretende eh bildu se abra paso en la sociedad no puede ser por lo tanto esos discursos que usted llama duros

ante la mentira de los servicios auxiliares de eta tenemos que defender

al menos los grupos políticos aquí presentes democráticos la verdad de los hechos la dignidad de las víctimas del terrorismo y en fin no caer en las mentiras

reflexionen y voten en contra de esta iniciativa eskerrik asko maneiro jauna bai

así que vale

usted ya ha debatido si no le gusta lo que los demás décimos de usted lo siento a nosotros tampoco nos gusta

onartzeko eskerrik asko gracias de nuevo señora presidenta en un debate
todos tenemos que escuchar cosas que no nos gustan y nos aguantamos no por eso pedimos la palabra para tener otra vez posibilidad de rebatir contra quién dice algo que no nos guste y mire

durante todos los plenos que usted trae este tipo de iniciativas diciendo mentiras

el pasado porque usted cree que una mentira mil veces repetida acaba convirtiéndose en verdad y no es así eta fue una banda

es una asesina y es una absoluta injusticia que solo haya cumplido un año por cada uno de esos asesinatos una injusticia y eta no era solo quien pegaba el tiro y eta no era solo el que ponía la bomba eta era mucho más que eso mucho más que eso pero es verdad que durante mucho tiempo no hubo leyes suficientes para hacer frente a eso

y hubo que dotarse de leyes de la misma forma que ahora nos estamos dotando de leyes de modificación del código penal para que se haga justicia

aquí si no le gustan los servicios auxiliares todo ese conglomerado societario a ver si eso le gusta más ese holding no tenía ningún reproche penal y aquí se ha dicho

los postulados en esta cámara por qué por que estaba en una institución democrática eso no es ser demócrata como no es ser demócrata poner en unos estatutos

muchísimo más muchísimo más y ustedes

lo que traen porque no la entienden y siguen sin entenderla

para atacarla siguen sin entenderla y siguen sin condenar sí y ustedes intentarán mil veces decirnos falsear ese pasado y nosotros mil veces se lo recordaremos y si les duele

les ha dolido durante mucho tiempo la falta de libertad que eta ha tenido sometido a este país

las personas que tienen en los cementerios o sea que si no les gusta lo siento se aguantan y usted hablaba de separación ya le digo cómo va a entender usted la separación de poderes

plenamente democrática y ustedes no entienden la democracia si por no entender no entienden ni los debates de esta cámara

si por no entender no entienden ni tan siquiera eso y ustedes se permiten el lujo de hablar de derechos humanos de verdad

de quien vulneró los derechos humanos durante mucho tiempo en este país entonces podrán venir a dar lecciones a los demás mientras tanto se lo he dicho antes

y señor egibar de verdad hoy es un día triste

no porque vaya a salir esta resolución no porque aquí la separación de poderes no importe no es un día triste porque ustedes han cedido ante estos señores

ustedes es verdad que durante mucho tiempo no han hecho mucho por acabar con eta o mejor dicho para que no se me enfade todas las acciones que se tomaban para acabar con eta ustedes les ponían pegas han puesto pegas durante mucho tiempo a la detección de los comandos

porque no era el momento como si la justicia tuviera que depender de si es el momento o no es el momento

sea el momento o no sea el momento se le detiene porque eso es la democracia cuando se aprobó la ley de partidos que ha devenido como un instrumento fundamental señor egibar fundamental

eta está derrotada porque no lo han abandonado ellos porque hayan llegado a no sé qué reflexiones no

la ley de partidos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado esos han derrotado a eta y yo sí voy a hablar de eta

es que hemos dejado mucho sufrimiento en el camino para poder llegar a esa derrota y usted habla de la ley de partidos que en este contexto pero oiga si cuando se aprobó no había contexto

eta estaba matando y ustedes la ley de partidos les pareció nefasta votaron en contra ahora ha habido una evolución

y para estos señores no mire yo ya le digo es una desgracia me parece

triste porque ustedes lejos de ir hacía adelante en el camino

un pasado común han preferido claudicar

sobre las sentencias judiciales cómo no se puede opinar incluso se puede fijar posición lo que no parece que sea adecuado

inadecuado es que se tomen decisiones en contra de ellas en parlamentos como parece que va a hacer usted con su voto

la iniciativa de eh bildu porque lo que pide la iniciativa

dictadas por decisiones judiciales de tribunales y por lo tanto usted no está opinando

usted va a votar en contra de las decisiones

tribunales de justicia legítimos y eso simplemente es ignorar la separación de poderes y no asumir que vivimos en un estado democrático y de derecho

condenamos todas las vulneraciones de derechos humanos todas incluidas las que han sufrido lo que se ha llamado

para repararlas y darle amparo por cierto como hemos empezado a hacer desde que estábamos en el gobierno y como ahora no tiene oportunidad yo le emplazó a usted o a cualquiera de los portavoces de su grupo

digan que ustedes rechazan repudian condenan todas las vulneraciones de derechos humanos incluidas las de eta porque cuando eso ocurra seguramente podremos avanzar mucho

finalizarán en esta cámara creo que usted no puede trasladar a los demás la responsabilidad de lo ocurrido en este país y mucho menos

porque la responsabilidad de lo que les ocurre es fundamentalmente de ellos y de ustedes me explicaré

el mundo de batasuna en vez de plantear durante muchos años desafíos a la legalidad apoyo justificación y amparo al terrorismo hubieran tomado la decisión de desarrollar política de forma legal o apostar cuando fueron ilegalizados como hicieron después por convertirse y constituirse en una organización legal respetando todas las reglas de juego incluida la ley de partidos muchas cosas

se hubiera evitado mucho dolor y mucho sufrimiento en este país pero en todo caso me va a permitir que les lea

porque es muy clarificador a ver si usted empieza a aplicarla cuando interviene en esta tribuna

rechaza firme e inequívocamente todos los actos de violencia y terrorismo y a sus autores

las diferentes formas de manifestación de la violencia y el terrorismo tal y como legislativamente han sido definidas en los diferentes apartados del artículo nueve de la ley de partidos sí de la ley de partidos dicen ustedes rechazan a quienes fomenten

conceptual o cobertura ideológica de los mismos rechazo

y organizativa con la violencia con las formaciones e instrumentos políticos que han sido ilegalizados por razón de esa convivencia así como cualquier manifestación

desarrollará su actividad desde el rechazo a la violencia como instrumento de acción política o como método para lograr objetivos políticos cualquiera que sea su origen o naturaleza rechazo que abiertamente y sin ambages incluye a la organización

el día que usted suba aquí y en sus discursos sea coherente con

que forman parte del acta fundacional de su partido algunas cosas y algunos debates se evitarán en esta cámara y el día que todos ustedes en la práctica diaria no solo en el papel asuman todo esto seguramente muchas cosas cambiarán en este país

nosotros sobre las distintas cuestiones tenemos posición y también porque coincide en el tiempo sabrá que en todas las instituciones

en todas las instituciones en las que ha habido necesidad de posicionarse en torno al macro sumario

con la apreciación que a los efectos también la señora llanos formulaba el error que supone etcétera etcétera le quiero decir que cuando esto se produce las detenciones hace cuatro años a los tres días no solamente

en contra a diferencia de las posiciones manifestadas por rubalcaba

el lehendakari lópez o el consejero ares o el presidente

que decían literalmente que los allí reunidos y posteriormente detenidos estaban en clara combinación con eta para buscar la fórmula política

y era evidente que la dirección era justo la contraria

que lo mismo que algunos alimentan determinadas tesis también hubo quien pensaba en aquel momento que quien actuaba de aquella manera igual lo que pretendía era

cerrarla para encontrarse de nuevo en un esquema político militar y

por lo tanto no hace falta darle más vueltas por eso decía que es posible que todos estemos de acuerdo en el objetivo que se ha conseguido que eta cese definitivamente

insiste en la condición de organización derrotada pero claro el derrotado militarmente cuando se lleva esa esfera y resulta o victorioso electoralmente o victorioso políticamente claro eso no cuadra

sabe señora llanos señor ares dónde está la clave de muchos de los despropósitos que de la mano ustedes han desarrollado durante tanto tanto tiempo en el pacto antiterrorista sí señor ares sí sí

al partido nacionalista vasco y a ea nos sometieron a una prueba de calidad democrática porque no superábamos los mínimos para entrar en un marco democrático aquí se determinan determinadas cuestiones desarrolladas y voy a citarles una por si les suena por lo de la sentencia

saben ustedes lo que dicen qué es lo que aplicaron más allá de iniciativas

la ley de partidos políticos vino como consecuencia a otra circunstancia fue la derrota electoral en las autonómicas de aquí pero sabe lo que dicen ustedes sobre la política penitenciaria dice

la política penitenciaria forma parte de la estrategia de persecución contra las bandas terroristas y por tanto se sitúa en el marco de acuerdo entre ambos partidos con el gobierno

resocialización o reinserción no estrategia de persecución de las bandas terroristas claro y se creen

que haber barkatu que estrasburgo no se iba a pronunciar isiltasuna

y claro se están produciendo escenarios no deseados pero los diseños políticos del pasado

entonces nosotros décimos más allá de lo que pueda ser la posición y lectura de cada cual décimos

y vencidos que vale que cada cual mantenga en su discurso nosotros décimos no puede haber impunidad no puede haber impunidad y tampoco una victoria electoral o una victoria que alguno considere política puede suponer coartada para

sobre su reciente basado político en lo que se refiere a responsabilidades políticas pero la cuestión que nos trae aquí hace cuatro años los detenidos entonces y encarcelados hoy estaban haciendo política

estaban presionando evidentemente a ese conjunto de la denominada izquierda abertzale bajo la estrategia esa político militar

y eso es una realidad no lo podemos negar es obvio entonces el escenario creado no es inmensamente más favorable

pues escuchados algunos discursos da qué pensar por eso pido

no perdamos los papeles tampoco en este ámbito parlamentario respetémonos respetemos la palabra pero el escenario es cualitativamente mejor y nos toca